comienzo por lo tanto con una reflexión general antes de pasar a algunos de los apuntes que he tomado en relación a las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios entre las críticas comunes o entre las o denuncias comunes que han planteado han trasladado la imagen de que el lehendakari tiene una actitud de autocomplacencia sobre la situación del país y del propio gobierno vasco

mi actitud política el tono de mi intervención tal y como ha subrayado el portavoz del grupo nacionalistas vascos ha sido de realismo realismo ante la situación que vive el país y de prudencia ante las incertidumbres y riesgos que tenemos por delante no voy a negar que he querido transmitir esperanza esperanza que necesita la sociedad ante esta ya demasiado larga crisis

y la creación de nuevos nichos económicos de oportunidad y algo tendrá que ver el gobierno y no solamente el gobierno también

o los acuerdos interinstitucionales el país está afianzándose en sus valores

sentimiento de pertenencia he dicho el país y no he dicho el gobierno que presido por lo tanto soy realista con la situación

y sigo convencido de que es un esfuerzo colectivo el que nos reclama

de compartir el trabajo de las instituciones y contar con la sociedad será posible avanzar en las intervenciones de esta tarde he tenido la impresión

como decía hay una serie de cuestiones comunes pero antes de eso intentaré centrar también lo que han sido los resúmenes de las intervenciones

a analizar los problemas y plantear si los problemas que he mencionado esta mañana tienen resolución concreta

a las ciudadanas y ciudadanos que están abandonados ha hecho una mención también a la pobreza energética me ha

de estar peor que hace un año que es obvio que la gente está peor

me ha acusado de incapacidad de insensibilidad

de que el balance que he presentado es lamentable de que los vascos tienen que irse al exterior ha centrado también una parte de su intervención en las críticas

en lo que es la situación de funcionarios públicos ha planteado la reforma del entramado institucional vasco la ley de territorios históricos la racionalización del sector público

señor maneiro mire sobre la racionalización del sector público se produjo una comparecencia

ha hablado de la corrupción cuál es mi pensamiento sobre la corrupción ha hablado

del nuevo estatus y me ha tildado de cobardía de equidistancia a la hora de hacer el planteamiento sobre el nuevo estatus como tercer eje de actuación que es el de este gobierno planteado ya en el debate de investidura me ha planteado usted o me ha apelado a que en el ejemplo de escocia se da una irresponsabilidad una

la soberanía está residida en los ciudadanos españoles el modelo territorial del estado también habría que debatirlo los procedimientos legales establecidos

mire ante lo que ha sido también su intervención en paz y convivencia

con su papel y esta mañana como en tantas ocasiones señor maneiro en tantas ocasiones en los plenos de control que tiene ocasión no sé si usted se satisface con que algún medio de comunicación le tilde

pero en cualquier caso en todas las intervenciones

da la impresión de que no me ha escuchado y pone en mi boca cosas que no he dicho cosas que no he dicho ni me ha escuchado y no ponga

me critica usted por cosas que no he dicho me critica porque no me dirijo directamente a los ciudadanos

y usted ya se dirige a los ciudadanos y ciudadanas usted ya se dirige a los ciudadanos y ciudadanas

a ver qué les parece a los ciudadanos y ciudadanas el recorte de autogobierno que usted plantea

usted les pregunta a los ciudadanos y ciudadanas qué es lo que les parece la devolución de la competencia de educación que usted ha planteado recientemente por ejemplo o usted

mire no se escude en el discurso de preocupación social y diga claramente que upyd plantea eliminar el autogobierno vasco eliminar la autonomía vasca

pues mire le alabo el gusto le alabo el gusto que le vamos a hacer

he planteado una política autocrítica y sobre todo realista soy el primero en reconocer la gravedad de la situación que estamos atravesando

he insistido en la cautela y la prudencia he querido poner el acento y lo vuelvo a hacer en las personas más desfavorecidas realismo seriedad

y señor maneiro ante esta denuncia de autocomplacencia reivindico sí una mirada en positivo

en euskadi en sus personas en sus empresas y en sus instituciones y confianza fundamentalmente en el trabajo concertado nosotros tenemos

de manera concertada con muchos sectores de la sociedad vasca trabajando poniendo las bases de la euskadi del futuro pero al mismo tiempo construyendo

que permita paliar los efectos demoledores de esta crisis no podemos señor maneiro ni vamos a caer ni vamos a ser autocomplacientes

creo que de su intervención también y de otras intervenciones merece la pena realizar algunas puntualizaciones las personas paradas en euskadi

hace un año eran ciento setenta y tres mil la economía vasca crece un uno por ciento

el uno coma dos por ciento creo que es de justicia reconocer estos datos y no son datos falsos señora mendia son datos de los estudios de economía vasca desde enero a septiembre de este año esta es la base que permite una mirada en positivo comparto

portavoces parlamentarios que la prioridad del país la principal es el empleo ahora bien que quede claro

las graves secuelas de más de un lustro de crisis no las vamos a poder solucionar ni en un año ni en dos

no parta de este principio de realidad y se quiera escudar en las críticas por los pocos efectos que puedan tener determinadas políticas promovidas por este gobierno acordadas con partidos políticos acordadas con instituciones concertadas con sectores sociales

en la realidad y yo creo que el ejercicio que he planteado esta mañana es una muestra como decía insisto el portavoz del grupo nacionalistas vascos de realismo y no de autocomplacencia señor maneiro mire

de falta de liderazgo que también se ha planteado en otras ocasiones y también hoy que podría derivarse también en una identidad o en una imagen de que es un gobierno sin rumbo el gobierno vasco de que es un gobierno sin contenido yo insisto

y es un programa de gobierno evaluable es un programa de gobierno contrastable públicamente por lo tanto el gobierno tiene plan y tiene rumbo

el rumbo está escrito remitido a este parlamento y publicado en internet

claramente a donde vamos decía esta mañana e insisto y lo demostramos con hechos concretos con contenidos y voy a insistir programa de reactivación económica

acuerdos también en el logro del cien por ciento de transparencia internacional en la garantía de las políticas sociales subvención del copago farmacéutico

centros de fabricación avanzada en energía y aeronáutica estrategia de especialización inteligente ris tres plan de internacionalización empresarial concesión de avales públicos a proyectos empresariales apoyo a la exportación plan de innovación turística planes locales y comarcales de empleo con más de mil trescientos actuaciones

de primera experiencia laboral a las personas jóvenes apoyo al sector agroalimentario becas global training plan de industrialización para favorecer

el plan vasco de emprendimiento junto con las diputaciones forales el plan de salud el plan estratégico de seguridad dos mil dieciséis la estrategia de innovación en el sector público

y con todas las acciones departamentales han marcado la acción de gobierno una acción insisto evaluable con la posibilidad de saber del grado de ejecución

acciones y actuaciones de este gobierno begira enpleguaren lehentasuna dela eta argi daukat

enplegua enplegua eta enplegua behin eta berriz errepikatuko duguna el ochenta por ciento de las actuaciones de este gobierno que he leído

una prueba más gráfica de que esta es nuestra prioridad de que la prioridad fundamental de este gobierno es el empleo creo sinceramente que acusar al gobierno de no hacer lo suficiente es injusto y es incierto reitero también cuál es el compromiso de este gobierno

apoyar a la empresa para que creen empleo y para tener futuro económico la internacionalización la innovación la tecnificación y los nuevos sectores el apoyo a la industria y los sectores de futuro la energía la fabricación avanzada las biociencias y salud

a fin de año el plan de ciencia tecnología e innovación saben ustedes que se ha aprobado lo he dicho esta mañana también el plan ris tres de estrategia inteligente saben ustedes que se ha creado también se ha constituido el consejo vasco de ciencia tecnología e innovación

que se ha constituido también el comité científico asesor consejo vasco de ciencia tecnología e innovación que por primera vez incorpora también representación

existente hasta el momento no voy a minusvalorar la tragedia del desempleo una sola persona parada ya es una tragedia pero todo se debe plantear en sus justos términos y los justos términos es que insisto

en agosto del año pasado dos mil trece había ciento setenta y tres mil seiscientos sesenta y siete personas paradas

nuestro compromiso está claro creación de empleo neto a partir del año dos mil quince

al inicio de la legislatura lo he dicho esta mañana lo reitero el partido popular

de liderazgo en la acción la referencia a la empresa el acuerdo social lo ha puesto en cuestión si este gobierno lo está trabajando

cual fue el esfuerzo que el gobierno vasco hizo el año pasado antes del siete de julio del año pasado

las organizaciones empresariales y con los sindicatos sabe que no es por falta de tesón del gobierno vasco ni por falta de implicación del gobierno vasco

responsabilidad del gobierno y sabe que a pesar de todo a pesar de que no se alcanzó un acuerdo el día limite cuando cuarenta y ocho horas antes casi teníamos el acuerdo y no lo fue por no por responsabilidad del gobierno vasco

en la necesidad del diálogo social y no solamente insistimos en la necesidad del diálogo social

de manera bilateral hemos tenido reuniones con agentes sociales con organizaciones empresariales y con sindicatos conjuntas

nos han solicitado que no abordemos todavía lo que pueda ser un ámbito de diálogo social porque también entre los agentes sociales hay muchas cosas que aclarar entre ellos mismos pero es vocación de este gobierno insistir en la necesidad de diálogo social y en eso estamos en eso estamos en estos mismos momentos

denbora guztia madrilera begira ez yo sí le pido a usted señora quiroga coraje en todas las cuestiones que dice que defiende para euskadi

ojalá que lo que dice que defiende para euskadi fuera verdad ojalá que lo que dice que defiende fuera que lo hace verdad ya usted aquí en el partido polular del país vasco ya ante el partido popular español o ya ante el gobierno español

que usted ha planteado defienda por ejemplo con nosotros en madrid el avance del tren de alta velocidad defienda por ejemplo con nosotros en madrid foronda hache veinticuatro defienda con nosotros por ejemplo en madrid

o defienda por ejemplo con nosotros en madrid en el debate que va a tener lugar el próximo siete de octubre en el congreso de los diputados la integración de treviño desde lo que es el respeto a la legalidad el respeto a la legalidad y la constitución artículo ciento cuarenta y uno punto uno de la constitución

al artículo ciento cuarenta y uno punto uno de la constitución y defender en el congreso de los diputados por ejemplo lo que es la reivindicación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de treviño

defienda a euskadi mire habla de rebeldía rebeldía es

después de treinta y cinco años rebeldía es revindicar el cumplimiento de una ley orgánica el estatuto de autonomía

en el año mil novecientos setenta y nueve yo creo que es solo cumplimiento de la ley y es por lo tanto

son los partidos con responsabilidad de gobierno español que han existido y existen que no cumplen treinta y cinco años después con una ley orgánica el estatuto de autonomía de gernika defiende usted conmigo en madrid

efectivamente nadie puede negar que hemos avanzado en el autogobierno en relación a lo que era

pero nadie puede negar que las expectativas que había generado son defraudadas

defraudadas una y otra vez por los partidos con responsabilidad de gobierno en el gobierno español mire usted ha hecho referencia a esas cosas que dice que defiende en euskadi

como es el concierto económico se ha arrogado usted que el partido popular del país vasco defiende el concierto económico me puede decir usted cómo defendió el partido popular del país vasco el blindaje del concierto económico en las cortes generales del estado

cómo lo defendió teniendo que ausentarse alguno de sus representantes para no votar teniendo que ausentarse

me puede decir usted qué hace el partido popular del país vasco realmente efectivo ante sus socios de partido de otras comunidades autónomas

y yo he planteado señora quiroga esta mañana que no es necesario ya porque estamos mirando al futuro

abramos una nueva etapa y yo le planteo tiene usted un proyecto para euskadi me bastaría con que el proyecto que usted pudiera plantear para euskadi fuera

y que se comprometiera a ellos con el gobierno español

señora quiroga que no confronte euskara con las ayudas sociales como ha hecho sobre este particular me referiré más adelante

en este punto del deseo de confrontación del euskara con las ayudas sociales precisamente

euskadi es un ejemplo de normalización lingüística y euskadi es un ejemplo de protección social por lo tanto

con las ayudas sociales se han planteado

recortes presupuestarios recortes yo creo que esta mañana insisto en ese ejercicio de responsabilidad en ese ejercicio de hacer ver

responsable hemos dicho o he dicho que habrá crecimiento económico pero que aumenta la demanda de políticas públicas y sociales y tengo que decir que este gobierno vasco cumple escrupulosamente los objetivos de déficit y los objetivos de déficit y el compromiso de deuda pactado con el estado

y hay que reducir el déficit año a año hasta el déficit cero en dos mil diecisiete y es algo señora mendía que no lo ha planteado el partido nacionalista vasco

y el partido socialista obrero español en una reforma exprés de la constitución como tantas veces hemos dicho

aun así creo que es necesario decir que euskadi es la tercera comunidad autónoma

que tenemos sí una deuda elevada se ha hecho mención a la deuda del quince coma dos por ciento del producto interior bruto pero creo que es también de justicia decir que la deuda del reino de españa es histórica es el noventa y nueve por ciento del producto interior bruto señor maneiro sí por mucho que usted lo niegue casi el billón de euros

es seguir mejorando la eficiencia interna con la revisión de la arquitectura institucional y el redimensionamiento también del sector público empresarial otra de las cuestiones

entre las críticas en el ámbito de las políticas sociales capítulo de salud

porque entendemos que la sanidad pública es un pilar del estado del bienestar

siguen teniendo un acceso a una sanidad de calidad y los datos reales que yo quiero destacar en el día de hoy es que el presupuesto de sanidad el presupuesto del departamento de salud de este año ha aumentado desde los tres mil doscientos sesenta y tres millónes del proyecto de presupuestos de dos mil trece

actuales es el treinta por ciento del presupuesto del gobierno tenemos también el mayor gasto per capita del estado

ocupamos el tercer puesto del estado en el ranking de calidad sanitaria

osakidetza tiene veintiséis mil trabajadores y trabajadoras y tengo que decir que no se ha reducido ni uno de los empleos fijos

se contrata menos personal interino sí

y no es una jornada impuesta por el gobierno vasco es más el personal de nuestro servicio

trabaja treinta y cinco horas menos que los del resto del estado y hay que decir también que sus condiciones laborales son mejores creo que es importante insistir también en lo que es la radiografía de lo que

de la salud que los hospitales vascos mantienen las listas de espera para operarse en torno a los cincuenta días creo que son datos como para tener en cuenta

es también la calidad en la prestación de esta política pública que es la salud mendia andrea

ha planteado usted que tenemos instrumentos recaudatorios suficientes y se ha centrado usted en lo que es el cumplimiento del acuerdo el acuerdo

mendia yo creo que tenemos que reconocer y decirlo públicamente además que tenemos una relación fluida

y los interlocutores del partido socialista de euskadi una relación fluida entre la interlocución del gobierno vasco con el partido socialista de euskadi y el partido nacionalista vasco que la tenemos nik uste dut

osoz betetzen ari gara y repasemos los compromisos compromiso para la reactivación económica y el empleo hemos aprobado el programa marco de seis mil cuatrocientos setenta y cinco millónes

en el que se incluye un plan de empleo de doscientos cincuenta millónes de euros y hemos desplegado ya más de un centenar de iniciativas y este ejercicio está dotado con más de dos mil millónes de euros

el uno de enero ha entrado en vigor la nueva normativa fiscal aprobada en los tres territorios se ha puesto en marcha un plan de lucha contra el fraude fiscal

por las haciendas de las tres diputaciones forales y el gobierno vasco hay acuerdo para acordar la armonización de nuevas figuras tributarias en la comisión mixta del concierto económico

arquitectura institucional el gobierno inició y creo que ante lo que han sido también críticas de otros grupos parlamentarios merece la pena insistir también en ello en el día de hoy inició su andadura con una reducción del veinte por ciento de sus cargos públicos con una reducción de su propia estructura nos hemos comprometido

el cuatro de febrero presentamos el informe sobre análisis y funcionamiento institucional planteo que tenemos un reto próximo que es el de la ventanilla única entre los tres niveles administrativos de euskadi y para eso también

experiencia piloto de servicios concretos tenemos un compromiso con el sostenimiento de los servicios públicos esenciales creo que

en una parte de la intervención esta tarde me he referido sobradamente a este aspecto insisto creemos

y lo reafirmamos los pactos son para cumplirlos no habrá oído de mí ni una sola queja

habrá oído hablar de que asumimos la responsabilidad

usted señora mendia ha cumplido su compromiso pero nosotros también nos gustaría ir más rápido insisto pero somos realistas y seamos realistas en unos meses que van desde la aprobación del acuerdo entre el partido nacionalista vasco

y estamos en septiembre del año dos mil catorce ha habido una reunión de la comisión de seguimiento a principios del mes de junio ha habido reuniones de trabajo a principios de este mes de septiembre

podemos estar satisfechos con lo que se va consiguiendo le emplazo también señora mendia a que sigamos utilizando las vías de colaboración abiertas para impulsar

y los proyectos en los que tenemos que profundizar además de lo que pueda ser también el debate sobre el futuro yo me quedo

oírla y es los socialistas siempre hemos estado en la construcción de este país me quedo con ello señora mendia

retos importantes retos como la ley vasca de educación retos como el pacto social retos como el plan de ciencia tecnología e innovación retos como el plan de empleo juvenil retos como el de la política industrial y la innovación

sigamos acordando sigamos defendiendo por el futuro del país lo que es la bondad de ese acuerdo yo le invito a que más allá de poner en solfa lo que pueda ser el grado de cumplimiento cuando es nuestro compromiso hágase usted valedora de ese acuerdo

nadie nos podemos arrogar de lo positivo o lo positivo que podamos estar haciendo no es mi pretensión desde luego y yo reconozco todo lo que haya sido un avance en estos treinta y cinco años no ahora solamente sino en estos treinta y cinco años

estoy de acuerdo en que han de verse reflejadas también algunas de las cuestiones en el proyecto de presupuestos para el próximo año dos mil quince por lo tanto

y el partido socialista tengo un compromiso con el mismo y creo que es necesario que reabramos la confianza

etorkizuna en relación al autogobierno que ha sido otra de las cuestiones bastante común en el emplazamiento a lo que es

mi posición la he expresado esta mañana la expresé en el debate de investidura

la he expresado en debates monográficos que han existido yo no soy quien presento un proyecto yo presento un modelo

el proyecto tiene que salir de lo que decida la ponencia de autogobierno la ponencia de autogobierno creada por ustedes y señor arraiz está bien que usted critique o tenga una impresión con respecto

pero admita también que en lo que ha sido el plan de trabajo de la ponencia de autogobierno ustedes también como grupo parlamentario han hecho sus planteamientos sus aportaciones

de la ponencia de autogobierno no plantee usted ahora una crítica a lo que es la ineficacia de la ponencia de autogobierno cuando ustedes han participado también de la elaboración de lo que pueda ser el plan de trabajo de esa ponencia de autogobierno yo planteo un modelo el modelo de diálogo acuerdo principio democrático principio democrático es al que me he referido en cuanto a la referencia de escocia señora quiroga insisto el referéndum de escocia se ha demostrado como un proceso democrático

no me venga usted con que si yo quiero la independencia o si el modelo de escocia o si el sujeto político yo me he referido públicamente también en lo que este referencia como modelo no la reivindicación porque las realidades son absolutamente propias

yo reconozco el valor de la institucionalización alcanzada en euskadi durante los últimos treinta y cinco años reconozco el valor y lo sigo reivindicando reconozco el estatuto de gernika como marco de autogobierno

que ha sido el que ha permitido un grado de desarrollo político económico y social de euskadi pero también le tengo que decir señora quiroga que estamos

por su incumplimiento reiterado y por el talante recentralizador del estado usted en su intervención inicial

el portavoz del gobierno o lo que desde el gobierno otros días se dice y sin embargo yo he venido aquí y he dicho o no he dicho lo que otras veces décimos en relación a españa pues le tengo que decir que efectivamente estamos decepcionados y estamos

por el incumplimiento del autogobierno por el talante recentralizador del gobierno español y acabamos de presentar noventa y seis alegaciones

por que es indudable que se ha alterado el pacto y es indudable que supone un autogobierno un ataque perdón al autogobierno vasco señora quiroga y a la capacidad de seguir generando bienestar de seguir generando bienestar que es para lo que queremos el autogobierno los nacionalistas del partido nacionalista vasco más autogobierno para mayor bienestar de las vascas y de los vascos no entendemos el concepto de autogobierno

o no sean nacionalistas vascos según

del gobierno español mire sobran por ejemplo el tribunal vasco de cuentas públicas el ararteko el tribunal vasco de la competencia eustat

y son organismos son organismos creados por ley de este parlamento por ley suprimirlos es

desarbolar el autogobierno son organismos creados por ley de este parlamento mire yo creo que

nos retrotrajéramos miráramos por ejemplo al inicio

en aquel momento y pensemos sí señora quiroga sí

que sobre la base de los principios económicos lo que busca es una recentralización

mezu batekin tengo esperanza creo en el país

creo en la capacidad que tenemos de salir adelante y ganar el futuro de hacerlo de forma compartida y con cohesión social reivindico que así lo hemos hecho

de crear empleo y de regenerar nuestro tejido económico para el entorno económico en el que vivimos creo que es necesario también

y resaltar las incertidumbres que existen en europa y que nos hacen ser cautelosos porque la cautela evita

porque las cosas efectivamente no están para sentirse satisfechos por todo ello reafirmo nuestros compromisos

el rigor económico el equilibrio de las cuentas en las instituciones públicas

institucional la ayuda del gobierno vasco para conseguir dicha estabilidad en la gobernabilidad institucional dar prioridad al empleo y a la economía

internacionalizarlas innovar buscar nuevos sectores de futuro seguir siendo solidario sobre todo con los que más están sufriendo la crisis creo que esta mañana he dado como dato de lo que es la cuantía que destinamos

y no por compararla con el resto del estado español pero creo que es también bueno que se reconozca lo que voces ajenas a la comunidad autónoma del país vasco ponen como ejemplo ponen como referencia lo que es el compromiso de las instituciones vascas no solamente del gobierno

garantizar por lo tanto los servicios públicos esenciales porque la educación la sanidad los servicios sociales son pilares como he dicho antes de la sociedad del bienestar

la ausencia de violencia insisto no puede llevarnos

soy muy consciente de que hace falta también una reivindicación y una exigencia a eta de su desaparición lo he planteado también esta mañana

desarme reconocimiento del daño injusto causado lo he planteado también insisto que la paz definitiva requiere la desaparición de eta y la normalización política y social

creo también en un nuevo futuro político para euskadi insisto también en el ejemplo que he puesto esta mañana de escocia escocia ha dado

en el principio democrático sí basado en el principio democrático atiendo lo que puedan ser propuestas de modificación de la constitución española pero de la misma manera que puedo respetar eso pido que se respete también cuando se ha planteado en la reforma de la constitución española la incorporación

de la sociedad vasca negada cuando se ha reformado la constitución digo que este parlamento tiene residenciado el proceso de debate dialogo

y somos siempre conscientes de que el futuro político de euskadi debe ser ratificado por la sociedad vasca y por último compromiso con la transparencia

pero tampoco admito que se confunda lo que haya podido ser un ejercicio fallido

corresponde a este gobierno ejercicio fallido que en todo caso también aun correspondiendo a gobiernos anteriores con responsabilidad del partido nacionalista vasco

por otras formaciones políticas con responsabilidad en el gobierno español no confundamos fallidos con casos de corrupción

en el compromiso con la transparencia y el buen gobierno tienen mi compromiso absoluto personal con la honestidad garantizando la transparencia es mi compromiso es posible que podamos como de hecho habremos cometido errores seguro en el gobierno

pero siempre será obrando desde la legalidad desde la legalidad revindicada y reclamada en todos los ámbitos desde la legalidad el buen gobierno

y la legitimidad democrática creo que es necesario concluir diciendo que hemos de seguir trabajando por este país por euskadi cada uno desde su visión

yo creo que hemos avanzado pese a los rifi rafes políticos que tenemos también en esta tribuna y en este foro parlamentario

en la cooperación entre administraciones publicas en ser capaces de acordar políticas y tenemos que compartir más nuestros puntos de vista nuestro diagnóstico sobre como afrontar los retos esenciales para el futuro de euskadi hace dieciséis meses tuve la oportunidad de intercambiar visión

con las y con los responsables de todos los partidos aquí representados se han producido cambios en algunos de los partidos políticos o de los grupos parlamentarios aquí presentes en ese sentido creo que tenemos la necesidad de actualizar nuestras visiones y propuestas con las personas

y es lo que ofrezco a partir de la próxima semana

y abierto sobre el futuro de nuestro país mi actitud en estos nuevos encuentros será consolidar una relación constructiva para poder superar juntos los retos que afrontamos beraz jarrai dezagun

presidenta señor lehendakari comprenderá que es usted el lehendakari y comprenderá que los grupos de la oposición venimos aquí a pedirle a usted cuentas por los resultado que haya podido en relación a la solución de los problemas fundamentales de la ciudadanía vasca no soy un palmero que vengo aquí a aplaudirle a usted soy

oposición contundente para pedirle cuentas a usted y en relación al programa político de upyd

y además usted en fin miente en relación a este programa pero en todo caso vayamos a analizarle expresamente a usted porque usted

y por lo tanto es el máximo responsable de los problemas que existen actualmente en la sociedad vasca y si efectivamente durante todo este año básicamente no ha solucionado ningún problema

y se lo recordemos usted habla efectivamente de planes que se han puesto en marcha

de estrategias de consejos yo le pregunto por los resultados obtenidos en todo lo que se refiere a la situación económica en la que se encuentran miles de ciudadanos sí

hace dos años y en todo caso señor lehendakari se siente usted satisfecho de esta situación se encuentra usted satisfecho de que tengamos a día de hoy más de ciento sesenta y nueve mil personas

he mentido yo en algo he trasladado algún dato que sea falso no es cierto que la pobreza se ha incrementado durante el último año no es cierto que la pobreza infantil se ha incrementado durante el último año y lo mismo con la pobreza energética

y efectivamente y el señor egibar ha venido a hacer básicamente lo mismo ha venido usted a comparar la situación de euskadi con la situación del resto de comunidades autónomas su obligación es en todo caso observar la evolución de euskadi

el último año ese es el ejercicio que usted tiene que hacer no insistir permanentemente en que estamos mejor que el resto de comunidades autónomas porque por cierto aquí

inferior que en el resto de españa y en todo caso me da igual yo lo que observo son los datos relacionados a la situación de miles de ciudadanos vascos

ha mostrado ser un lehendakari capaz de resolver los problemas de los ciudadanos y por eso le he acusado a usted de incapacidad por no haber resuelto esos problemas que a la vista están y a los datos me remito y le he acusado a usted de insensibilidad porque no ha señalado y no

a día de hoy hay miles de ciudadanos que se encuentran en peor situación de la que se encontraban hace un año y esto son datos absolutamente reales por lo tanto

fundamentales de la sociedad vasca y cómo vamos a confiar en usted si no plantea ni una sola de las reformas que nosotros consideramos indispensables

no ha llevado a cabo ni ha impulsado ninguna de las reformas que euskadi necesita cómo piensa usted que nosotros vayamos a confiar en usted para los próximos años absolutamente imposible no ha planteado ni una sola reforma en lo que se refiere institucional ni una sola medida para acabar con las duplicidades y las ineficiencias que este entramado institucional provoca la ley de territorios históricos

ni una sola medida para reformarla ahora la señora mendia anuncia que en los próximos meses si el gobierno no lo hace traerá una propuesta para la reforma de la ley de territorios históricos correcto interesante interesante que el grupo socialista haga ahora lo que no hizo mientras gobernaba pero en todo caso ojalá podamos debatir de la reforma

históricos fraude fiscal dónde están los resultados supuestamente obtenidos por ese plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal porque ha pasado ya un año desde que ustedes acordaron la elaboración de un plan conjunto que tardó tiempo meses en ponerse en marcha y en todo caso los resultados cómo no vamos a recordárselo a usted dónde están los datos de ese plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal que se iba a presentar en este parlamento y que todavía no se ha presentado y el sector público societario sigue sin reducirse opacidad absoluta no sabemos exactamente a qué se dedican esas empresas qué personas están contratadas qué es exactamente

opacidad absoluta decenas y decenas de empresas públicas y semipúblicas muchas de ellas convertidas en agencias de colocación para colocar a su gente inmensa opacidad inmensa opacidad

exigiendo que todas esas empresas públicas en fin sean más transparentes de lo que son además de que deberían ser muchas menos de las que existen ni una sola medida en relación a esta cuestión señor lehendakari no habla usted de corrupción

sobre la cuestión pretende acaso tapar la corrupción o las corruptelas usted únicamente ha citado el tema relacionado con epsilon e hiriko ese derroche de dinero público a favor de unos pocos usted habla de proyecto

a beneficio de personas cercanas al partido nacionalista vasco esto usted no lo puede negar un proyecto fallido en beneficio de determinadas personas afines al partido nacionalista vasco en todo caso tenemos a un gobierno que está siendo investigado por la justicia

qué le parece a usted qué tiene que decir en relación a esto no ha hablado tampoco de la cuestión

investigando al gobierno vasco por financiar ilegalmente a medios de comunicación afines esta es la realidad de los hechos tampoco ha hablado nada

donde estaban dos personas afines al partido nacionalista vasco y que según todos los indicios han venido cobrando dinero público sin

ni ha hablado del caso de miguel ni ha hablado ni ha citado situaciones de presunta corrupción en el ámbito municipal y que afectan a cargos del partido nacionalista vasco no le parece a usted que la corrupción y las corruptelas son un asunto relevante

debería al menos decir algo más si recordamos que efectivamente el fiscal superior del país vasco hace apenas dos semanas ha dicho que en euskadi sí hay corrupción cómo vamos a confiar en un gobierno que ni siquiera habla de corrupción cómo vamos a confiar en que usted mueva un dedo para acabar con la corrupción

niega que exista en fin ya digo no resuelve los problemas a los hechos me remito a la situación de miles de ciudadanos vascos

viven peor miles de ciudadanos vascos viven peor que hace cómo vamos a confiar en usted y cómo vamos a confiar en usted si nos amenaza con la ruptura la división y el enfrentamiento

al escocés esto es lo que supondría la independencia el enfrentamiento y el empobrecimiento de la sociedad vasca esta es la realidad

nos mostraba el programa del partido nacionalista vasco nuestro objetivo es que ese programa no se cumpla y yo le puedo enseñar también

la legalidad vigente la constitución española que evidentemente puede cambiarse pero a través de los procedimientos establecidos y en todo caso nosotros ante ese programa

del partido nacionalista vasco nosotros lo que vamos a defender siempre va a ser el interés general de la ciudadanía

al egoísmo de todos los nacionalismos esto es lo que nosotros vamos a seguir defendiendo

usted habla e insiste y habla de acuerdos de concertación de diálogo de pacto es posible

y que tanto el partido socialista de euskadi como el partido popular le aprueben los presupuestos yo creo que el objetivo no es tanto llegar a cualquier tipo de acuerdo

los intereses de los distintos partidos políticos sino impulsar esas reformas pendientes para atender mejor a la ciudadanía vasca nosotros a esto nos comprometemos a seguir siendo oposición y oposición contundente no vamos a ser palmeros vamos a exigir cambios vamos a exigir que se pongan en marcha todas esas medidas que venimos reclamando y que en los últimos años no se han puesto en marcha y para concluir señor lehendakari usted no resuelve problemas

y por eso le repito lo que le decía en mi primera intervención ha hecho gala de una inmensa incapacidad y de una enorme insensibilidad y ciertamente
no sé qué es peor quizá sea peor lo segundo gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren bozeramailea den

gracias señora presidenta mire lehendakari

a mi grupo le queda claro que usted ha venido a este debate con el único propósito de no meterse en ningún charco político de seguir interpretando un papel que le interesa políticamente a su partido a esperar que la tormenta de cataluña escampe y después ya veremos

política de su gobierno yo sí quisiera hacerle referencia a alguna de las cosas que usted ha dicho voy a empezar

yo le reconozco que esa votación no me gustó no me gustó

me lo compensó cuando de verdad estaba en peligro el concierto económico y se hizo la defensa que se hizo en bruselas porque eso es de verdad

me conformo cuando las negociaciones que usted sabe que hubo respecto a la prórroga del concierto económico ustedes estaban dispuestos a dejar caer el concierto económico y fue el gobierno del partido popular el que tuvo que unilateralmente prorrogar la vigencia del concierto económico eso es lo que a mí me vale eso es lo que yo creo que demuestra que realmente el partido popular

por eso no lo voy a permitir en este sentido que genere ninguna duda sobre la defensa que hace mi partido del concierto económico

también quiero decirle algo claramente usted ha deslizado con malicia

nosotros queríamos contraponer el gasto en euskera a las ayudas a la conciliación no no nos haga trampa usted ha hablado esta mañana del rigor y de priorizar en el gasto

dónde está usted priorizando ese gasto por qué hay dinero seguro para determinadas partidas y para otras

se acaban como las partidas de ayuda de la conciliación de la vida familiar y laboral como las ayudas de emergencia social usted cree que es justo lo que han hecho con las familias con hijos con discapacidad

si sus hijos iban a contar con ayudas para ese apoyo que necesitan en los colegios que no lo han sabido hasta el último momento que ha empezado el curso escolar

cuánto es ese montante cuánto dinero es eso sabe por qué no le puedo decir

cuánto dinero destina el gobierno vasco a esas ayudas hemos tenido que pedir amparo a la mesa porque en esa transparencia

todavía no nos han contestado yo le hablo de hechos le hablo de realidades

unas partidas no se discuten de su presupuesto y hay otras que sí entran en discusión

para las aes no pasa nada eso es priorizar el gasto

luego son muy exigentes con todos los demás yo le he escuchado esta mañana cómo usted explicaba que les gustaría que las inversiones fueran a otro ritmo que esa reducción drástica de las inversiones no se hubiera tenido que producir pero que no había dinero para todo

y eso sí el tren de alta velocidad tiene que ir a los ritmos porque aunque no haya disponibilidad presupuestaria resulta que ahí no vale ese argumento por qué si le vale a usted ese argumento esta mañana para excusarse

de que las inversiones no van al ritmo que le gustaría pero eso no le sirve para otros al menos hay que ser un poco justos y si estamos hablando de realidades

usted siempre me echa en cara lo mismo es decir yo creo que hay temas que son recurrentes yo creo que en ese intento de hacer ver que el partido popular lo único que puede aspirar o lo único que puede decir es qué pasa con foronda qué pasa con el tav qué pasa con el cupo

que es necesario que se avance en todo eso pero no quiera hacernos ver como que nosotros somos los delegados del gobierno de españa en euskadi

nosotros tenemos un proyecto para este país un proyecto que yo le he expuesto esta mañana y usted me pregunta a mí qué

lo que nos hubiera gustado es que usted hoy aquí hubiera venido

cuál es su proyecto lehendakari cuál es su proyecto porque no sé si he entendido que usted se conformaría ahora con el desarrollo del estatuto

no lo sé es que usted lo ha dicho aquí me lo ha preguntado a mí no se lo pregunto yo usted se conformaría con el desarrollo estatutario no entonces porque no viene aquí

al parlamento donde nos están viendo todos los vascos y dice claramente este lehendakari qué proyecto político tiene para euskadi

no lo puede exponer porque es el de la independencia y tiene que responder a una serie de preguntas

o sabe que no le interesa para nada la respuesta que tiene que dar pero mientras tanto hoy usted aquí se pone de perfil no nos dice que es lo qué quiere hacer

otra vez con el puño en alto por qué

porque necesitan mantener esos sentimientos arraigados para qué para mantener el poder

por eso van estableciendo estrategias en las que van un paso para atrás

para mantener el poder nada más pero mientras tanto lehendakari yo creo que la historia la ha puesto en un momento

al pnv se le está viendo el plumero porque este momento usted sabe que requiere de acciones requiere de la toma de decisiones y usted sabe que eso supone un desgaste para aquellos gobiernos que tienen que afrontar

que tienen que gobernar en estos momentos y ustedes no están dispuestos a asumir esos riesgos y el problema no es que ustedes no estén dispuestos

y que eso pueda tener consecuencias para ustedes el problema es que está ya teniendo consecuencias para la sociedad vasca porque nosotros es verdad que hemos creado empleo pero cuéntelo todo

vamos mucho más lentos cómo se puede entender eso usted no ha definido aquí por dónde vamos a crecer

cuál es su política industrial sabe lo que ha estado haciendo durante todo este tiempo

apagando los incendios pero siempre por detrás nunca por delante de las situaciones que se han producido en euskadi usted sabe que se ha pasado por situaciones muy difíciles qué ha hecho el gobierno vasco colocarse de perfil

cuando ya las cosas estaban ya prácticamente resueltas o ya no había nada que hacer

liderazgo le pedimos que dé la cara que arriesgue porque lo necesitamos los vascos mire yo voy a terminar diciéndole

a arrimar el hombro estamos dispuestos a ayudar

el problema es que después de este debate de hoy

es necesario los acuerdos y que los acuerdos son buenos claro que sí el problema es que

de ponerse de perfil usted mismo crea una incertidumbre que no es buena para esos acuerdos porque no sabemos

en esos acuerdos y mientras usted no se defina va a ser muy difícil porque el problema es usted lehendakari su ambigüedad

no termina de decir por donde lo va a llevar y se necesita estabilidad en un momento de incertidumbre como usted bien decía esta mañana se necesita

estabilidad lehendakari eso es lo que le pedimos y nos hubiera gustado que hoy aquí en el parlamento donde se tiene que hacer de cara a toda la opinión pública

no sé a estas alturas de debate cuántos ciudadanos seguirán conectados por la pantalla de su ordenador o de su televisión siguiendo un debate y unas intervenciones que el grueso de ellas la verdad es que no han ocupado

no creo que el derecho a decidir ni el nuevo estatus político ni siquiera la ponencia de autogobierno que podemos compartir todos

ha sido francamente decepcionante la falta de interés que han demostrado la mayoría de los portavoces de los grupos no voy a entrar en dimes y diretes

si quién dijo qué o quién dijo cuál yo me remito a la hemeroteca y los hechos lo que dicen es que ustedes decidieron entrar

que han demostrado tener una clara falta de diligencia a la hora de gobernar y a la hora de cumplir los acuerdos firmados esa es la verdad

la falta de capacidad que ha tenido el portavoz del grupo nacionalistas vascos para defender su labor

en favor del empleo y de la economía vasca ni una sola palabra para referirse a la gente que lo está pasando mal y no encuentra amparo en su gobierno y si no es capaz de defenderlo el señor egibar pues qué podemos pensar los demás que nos sentamos en esta cámara

el resumen es mucha enumeración de muchos planes pero a la hora de exhibir

y entiendo que mucha de la gente que se sienta en esta cámara y nos ve fuera echado en falta y también debo decir que ha sido usted previsible previsible porque también nos ha sacado los datos de la deuda

la deuda y el déficit público que el déficit de los ciudadanos parece que es así esa es su opción a mí desde luego me preocupan más las cifras de las personas que no llegan a final de mes me preocupan mucho más

y lo cierto es que hoy en euskadi las personas lo están pasando mal y es verdad que el gobierno socialista se endeudó pero el suyo también

tocan siempre el cielo presupuestario de aprobado por esta cámara han hecho casi el total de lo posible en este año solo en el primer semestre

lógicamente la pagaran los siguientes gobiernos y eso yo no se lo voy a criticar nunca nunca no me oirá a usted reprocharle la herencia de la deuda a otros gobiernos nunca pero sí me puede oír reprocharle que deje una herencia de pobreza

de no ayuda a las familias eso sí me va a oír reprocharle y usted recibió una herencia

pero también recibió una herencia de no recorte en los servicios sociales

de los planes anticíclicos de las políticas de investigación y desarrollo

y explicar por qué en el año dos mil diez en el año dos mil once y en el año dos mil doce usted que presidía el partido nacionalista vasco partido que gobernaba

y eso también hizo que el gobierno socialista tuviera que acudir más a la deuda pero desde luego creo que tendríamos que dejar

y vuelvo a decirle hay que priorizar y ahí en la priorización le invito a que lo haga

con la colaboración socialista nosotros firmamos con ustedes un acuerdo hace un año pero a quién compromete ese acuerdo a quien apela es a ustedes al gobierno nosotros hemos hecho nuestra parte queda de su mano el hacer lo que queda

pero de nada sirve si no sirven para cumplir el acuerdo y los acuerdos son para cumplirse como digo

ahora porque hay que recordarle que usted cuando llegó al gobierno y en los meses previos a llegar a usted al gobierno que estábamos en una situación de emergencia social yo creo que los datos económicos y los datos de pobreza y de como están las familias también dicen que estamos en una emergencia social por lo tanto no admitimos excusas y no le pedimos que no atienda a las obligaciones de la deuda ni muchísimo menos nuestro gobierno cumplimos de largo de largo el objetivo de déficit incluso dejamos un margen

puede acudir son públicos por lo tanto nosotros lo que le pedimos es que explique cuántos ingresos va a tener

es decir cuánto va a sacar del fraude fiscal porque ahora que están ustedes elaborando los presupuestos y ahora que vamos a tener el consejo vasco de finanzas en octubre tendrán que hacer ustedes una previsión

a plena potencia del acuerdo fiscal que aprobamos y que va a tener pleno efecto en el año dos mil quince ya hemos tenido un poco de efecto en el año dos mil catorce en el dos mil quince mucho más y todo eso todos esos números tienen que estar encima de la mesa con transparencia para poder destinarlos

y la incentivación económica por lo tanto

es que no aceptaremos propuestas de resignación lo dijimos cuando votamos en contra de los presupuestos

en el que se quiera proteger su gobierno para no hacer las políticas sociales y económicas que necesita este país usted eligió gobernar en minoría

los ciudadanos para salir adelante también recordarle lehendakari que el acuerdo que firmamos no es un acuerdo con vocación plurianual aunque tenga partidas plurianuales y aunque el acuerdo fiscal y tenga una vocación lógicamente de estabilidad plurianual porque si no al final no acabas si estás moviendo la fiscalidad

no acabas obteniendo los beneficios que son necesarios por lo tanto las manos las tenemos libres y el acuerdo no tiene una vocación plurianual

y con el tema del autogobierno el señor egibar y usted hablan de escocia y también de gernika la verdad es que me cuesta seguirles porque usted lehendakari a la señora quiroga le ha dicho que se daría por satisfecho con el cumplimiento del estatuto de gernika del mil novecientos setenta y nueve

y hemos viajado por otros países a lo largo de los últimos años en este parlamento y yo la verdad es que a mí lo que me sorprende como vasca y teniendo el estatuto de gernika encima de la mesa

aplicar por ejemplo la cláusula que está en el estatuto de preguntar a los navarros si quieren entrar a formar parte de euskadi por aquello del sujeto político y del derecho a decidir

el sujeto político y ustedes están hablando de un pueblo vasco

que no definen qué sujeto político en el ejercicio de un supuesto derecho para un proyecto que no concretan

es verdad que en el pasado aunque ahora reniegan de la constitución española en el pasado estuvieron ustedes en los debates constitucionales compartieron la constitución española aunque luego se abstuvieron

el reflejo del acta del congreso de los diputados de entonces los votos del partido nacionalista vasco fueron en contra del derecho

dijo que no quería ser trampolín para la independencia y que euskadi no se veía él comiendo berzas por lo tanto eso es lo que dijo el señor arzallus entonces

que si ustedes realmente quieren participar del cambio constitucional que más pronto que tarde se abordará en españa mójense y participen hagan ahí las propuestas

y ahí nos podremos encontrar pero desde luego que se mojen también sus diputados en madrid nada más y muchas gracias eskerrik asko mendia andrea

un acuerdo entre el pnv y el pse evidentemente respetable legítimo es un acuerdo que hasta el día de hoy al pnv le ha salido barato

que para el conjunto del país para su ciudadanía es una pérdida de tiempo es perder la legislatura porque no va a responder ese acuerdo a los problemas principales de este país como lo ha demostrado en este tiempo ahora parece que la actitud es la de subir un poco el precio no creemos tampoco que vaya a ser para tanto

de la estrategia político militar de eta que se nos empieza a hacer ya bastante cansino porque parece que cuando no hay nada más que decir volvemos a la estrategia político militar de eta

porque no es tampoco nuestra cuestión ematen du orain euskal herria ere ez dela independentea

los del puño en alto son de esta bancada según la internacional levantan una u otra y otros evidentemente

porque no son del puño pero dice usted que

no ha diseñado no ha perfilado cuál es la política industrial etcétera etcétera también me dice idoia mendia que no hemos hablado

que está sin empleo que está en el paro desasistida y hemos hablado de todo eso

qué países son los punteros los pujantes los vitales los mejor ordenados donde tendríamos que orientar si europa evidentemente sigue estancada y cansada

citado la manufactura especializada se ha citado la energía el transporte

el gobierno sí tiene diseñado hay una política industrial que persigue

y yo creo que se ha concretado ya en la acción de gobierno y también tendrá reflejo en el proyecto presupuestario quisiéramos más presupuestación

priorizando evidentemente como obliga la política baita ere se ha hablado

de escocia y de la crispación y de lo que divide y no divide

en quebec y allí no había ni una fractura social y en escocia no hay fractura social

ha compartido espacio electoral incluso con nosotros las explicaciones nos las daban conjuntamente no ha habido

la nación escocesa ha hablado y los periódicos decían el día de la votación dieciocho de septiembre habla la nación decide la nación y al día siguiente

yo sí conozco alguna sociedad fracturada sabe cuál es la española los dos partidos

de españa no se ponen de acuerdo en nada para nada saben para qué se ponen de acuerdo

política al pacto antiterrorista para hacer

una alternativa democrática orillando o desplazando al partido mayoritario o sea salvo para

no se ponen de acuerdo para nada y en nada esa sí es una sociedad crispada si el ejercicio democrático

a este pueblo y esta sociedad se asienta sobre bases de respeto

por qué va a haber crispación por qué va a dividir o sea el que quiere consultar divide y el que prohíbe une cómo es esto

porque un gobernante lejos de prohibir lo que tiene que atender es la respuesta de esa ciudadanía darle cauce primero no prohibir y atender lo que libre y democráticamente esa comunidad política ha podido decidir eso es lo que tiene que hacer si usted

es una falacia el derecho a decidir corresponde a todos los españoles bueno existe o no existe el derecho a decidir eta gero

aquello lo hicimos porque había un bien superior sozialistak esanda arrancar el alto al fuego de eta

luego alguien podría corregir que la paz tenía un precio

encima de la mesa las propuestas correspondientes y vamos a ver si podemos identificar entre todos si estamos de acuerdo o no

arantza quiroga en un artículo reciente reconoce que el pueblo vasco existe

mayor oreja decía depende depende para qué entonces si el pueblo existe

no podrá imponer su propia posición tendrá que negociar con alguien pero podrá determinar

cada vez que saca el debate de la territorialidad vuelve el conejo de la chistera que es la de el federalismo pero ese conejo ya lo conocemos

la forma que le quiere dar a ese proyecto federal y desde luego ya en su día pasqual maragall nos dijo olvidaros

incluido el asimétrico está orillado y enterrado por los nuestro

entonces ya veremos cuando conozcamos la propuesta de qué va a partir de ahí nosotros en el debate creo que en las formas como en el contenido no hemos intentado faltar a nadie ni el lehendakari por supuesto ni yo mismo y lo único que quería es en este momento que termina ya este debate ba lehendakariari esan bi urte pasa direla eta